presidenta buenos días de nuevo lehendakari miembros del gobierno señorías bien

comisión de derechos humanos compareció el explicando un interesante informe en relación con la atención socio sanitaria a la salud mental de las personas privadas de

datos un análisis de lo que había sido el trabajo de la institución que encabeza y bueno en ese sentido algunas conclusiones salieron de

hay que recordar que la sanidad penitenciaria se traspasó a la comunidad autónoma el uno de julio de dos mil once y desde luego desde esa

hay que reconocer en cómo está la sanidad penitenciaria la salud

y lo hemos visto en diferentes grupos de trabajo grupos de trabajo a veces formados por

instituciones penitenciarias y se ha trabajado y se sigue trabajando

sobre la integración sanitaria penitenciaria y

que destacar se ha avanzado mucho en lo que es utilización de osabide de la historia clínica

la telemedicina y efectivamente pues ahí están los avances y también el ararteko

se expresa en ese informe en ese sentido nosotros entre otras cuestiones lógicamente ahí está el informe

disposición de todos y no hay que repasarlo pero sí nos habíamos quedado con un llamamiento que hacía el defensor del pueblo

en relación con algunas de las cuestiones básicas que abordaba este

entre las recomendaciones del informe pues había una que está justificada y que el ararteko explica tanto en las conclusiones como en las recomendaciones como en lo que es el desarrollo de un informe potente e interesante vuelvo a decir

la implementación de un plan de sanidad penitenciaria por parte de osakidetza que permita atender de manera homogénea a las personas presas

así como ausencia de protocolos de coordinación y derivación a los recursos de la red comunitaria

importante es una recomendación que es lógico que la haga después de un análisis y que es lógico también que se pueda atender desde el departamento de sanidad desde

también dice que en lo que se refiere a la salud mental el plan de sanidad penitenciaria a de definir la interacción con el programa marco de atención integral a enfermos mentales en centros penitenciarios

de algunas mejoras y habla de que será preciso afinar los criterios de inclusión de las personas presa en el citado programa decía que resulta imprescindible la incorporación del programa marco

de la personalidad graves también entendía que era necesario no excluir del programa

por uso de sustancias también decía que resultaba

y penitenciarios que confluyen sobre la persona por ello deben habilitarse cauces permanentes de coordinación entre las y los técnicos de instituciones penitenciarias y el personal sanitario de osakidetza que interviene en el medio penitenciario

recomendable eso que se siga abordando ese análisis desde lo concreto y por eso entendemos que ha trabajado

y ahí están las cuestiones que manifiesta él decía en relación con

de la sanidad penitenciaria y algunos de los avances que se detectan

de un plan de sanidad penitenciaria por parte de osakidetza que permita atender de manera

eso es lo que habíamos dicho en la recomendación también que lo recoge en las conclusiones y decía y bajaba al detalle de una serie de puntos

diferencias en los criterios de atención se detecta la ausencia de protocolos de coordinación entre los equipos médicos de los tres centros penitenciarios

en la dotación de los distintos equipos no parece adecuado el uso de las unidades de custodia penitenciaria para la atención y valoración de las personas presas con trastorno mental siendo aconsejable que estos pacientes

a partir de la información que ofrecen los atlas de salud mental de gipuzkoa y bizkaia y en la confianza de que este tipo de herramientas se hagan extensivas al territorio alavés es preciso profundizar por parte

en el conocimiento exhaustivo de los recursos sanitarios de los que

también se refería a una presencia e intervención más estructurada intensa y uniforme de los profesionales también se hacía necesario reflexionar sobre la naturaleza de la

en prisión en términos generales y también parece que sería conveniente que se facilitase el acceso de los equipos médicos de las prisiones a los informes

parecía que podían ser analizadas algunos de ellos que hablan de la coordinación y que hablan de esa inexistencia de protocolos parece que en mayor medida o con mayor insistencia y por eso hemos presentado nosotros una proposición no de ley en la que entendíamos y queremos que el parlamento vasco inste al departamento de salud del gobierno vasco

que permita atender de manera homogénea a las personas presas con enfermedad mental

en los distintos centros penitenciarios que incidan en los criterios de atención las dotaciones de los equipos la confección de protocolos de coordinación y la derivación a los recursos de la red comunitaria

las sugerencias y las recomendaciones de un estudio especializado por parte de la institución del ararteko y

hemos visto y hemos conocido una enmienda de transacción en la que además de este tema de la redacción de un plan de salud penitenciaria en relación con las personas presas

en general de instituciones penitenciarias para nosotros ese es otro debate que tendrá su

otro debate a lo que es la cuestión puntual una vez transferida en su día la transferencia la cuestión de la sanidad penitenciaria pero bueno en la votación de la enmienda de transacción

en el primero pues no nos opondremos nos abstendremos porque eso forma parte de otro tipo de negociaciones que no serían las ad hoc en relación con esta

estamos hablando por tanto de un número de personas fallecidas

o enfermedad mental como es el caso que hoy nos ocupa y todo esto ocurre en instituciones que están en nuestro territorio pero de las que poco conocemos y sobre las que apenas tenemos capacidad de incidir es por eso

incluíamos un punto fundamental estamos hablando de la necesidad de completar cuanto antes

de manera que la atención a la salud mental de las personas presas

de ejecución penal propio no estamos planteando nada nuevo porque esta solicitud va en coherencia con acuerdos parlamentarios que ya se han adoptado en esta cámara y con la propia recomendación del ararteko este punto se ha incluido también en la enmienda transaccional que hemos firmado palabra por palabra tal cual estaba en nuestra enmienda a la totalidad y en este momento quiero agradecer la disposición tanto del señor orbegozo como de la señora roncal para llegar a un acuerdo y tengo que decir que ha sido tremendamente sencillo argi dugu

que padecen una enfermedad mental quedó claro que el abordaje de esta cuestión tiene muchas lagunas

coordinada articulando recursos personalizados para tratar a estas personas de manera integral

independientemente de donde estuviesen cumpliendo pena y si tan importante es la atención

dentro de la prisión no menos importante es la inserción social y sanitaria a la hora de la salida de prisión es fundamental por tanto que se pongan en marcha recursos

residenciales y que en la calle se haga el seguimiento oportuno para controlar la enfermedad y favorecer

sailburuok egun on denoi esta proposición no de ley trae consecuencia efectivamente de la comparecencia del ararteko en comisión mixta de salud y servicios sociales derechos humanos en la que nos explicó que había realizado efectivamente un trabajo de campo

entrevistado con presos con psiquiatras y con personal de las propias cárceles y como consecuencia

me han precedido en el uso de la palabra y que han señalado efectivamente determinadas carencias yo voy a hacer hincapié en otro aspecto que

que es las condiciones propias del cumplimiento de la pena

las penas que se cumplen en determinadas cárceles con determinadas condiciones pueden hacer que empeore la salud mental y en ese sentido

y de las competencias penitenciarias viene a corroborar que efectivamente las propias penas pueden ser motivo de enfermedad mental

esa propuesta de que las penas sean casi casi una venganza contra el que ha

o quizá de una propia salud mental previa no adecuada delinque esas penas esa

genera una enfermedad mental porque no es lo mismo tener unas penas adecuadas

y que intenten la reincorporación social que las que se utilizan como castigo y como venganza por haber delinquido eso por un lado la propia pena pero es que está luego las condiciones en las que se cumple esa pena la masificación de las cárceles

saludables para que la pena que tienen es privación de libertad no hace falta añadir penas complementarias

de que hay piscinas oiga no se les ha privado de unos mínimos vitales para que se desarrollen porque además las condiciones desfavorables

son siempre para los más vulnerables porque el que tiene recursos ya se trae recursos de fuera por lo tanto los recursos públicos que se pongan en las cárceles son para igualdad para facilitar la igualdad del cumplimiento de la pena

por tanto la transferencia de las cárceles de las competencias penitenciarias solicitan precisamente para mejorar esas condiciones de las cárceles para no empeorar la propia salud mental y yo

estamos de acuerdo en que efectivamente son necesarias ambas condiciones pactadas tanto la transferencia de las cárceles como mejorar pues

la coordinación sanitaria precisamente en una población que tiene un porcentaje de enfermedad mental mucho mayor que la población general por tanto nada más que

la aceptación de esta transacción e intentar impulsar para que el gobierno haga todo aquello que esté en su mano para mejorar estas condiciones

es decir a raíz de de la transferencia a la sanidad penitenciaria al departamento de salud del gobierno vasco

de los centros penitenciarios de nuestra comunidad autónoma eta

exijitzen duten hainbat patologiatan por lo tanto ha sido posible instalar una dinámica muy parecida a la que se puede dar

y avanzar definitivamente en las patologías que requieran una atención especializada u hospitalaria eta normalizaziorako

esto es gracias a la posibilidad de llevar a cabo las consultas a distancia por ejemplo citado anteriormente en lo referido a la telepsiquiatría a la atención telemática

los tiempos de demora son prácticamente nulos zentzu horretan gainera osasun mentalaren esparruan

eta erizainek lurralde bakoitzeko espetxean asistentzia eman ahal izateko asistencia que además es proporcional y ajustada a la prevalencia e intensidad de las patologías detectadas eta ez hori bakarrik

hay pacientes comunes a ambos circuitos bestalde baimen delako

forma parte de la estrategia de salud mental del sistema nacional de salud por cierto documento que

dentro del consejo interterritorial por todos los consejeros de salud de las distintas comunidades incluida la de euskadi entendemos que es justo por lo tanto destacar también

por la comisión de coordinación de la atención en instituciones penitenciarias

que establece los procedimientos sanitario administrativos en el medio penitenciario y que se ha convertido en un referente para otras instituciones un manual que es público y que podría considerarse perfectamente como un plan aunque no tenga esa denominación

en su apartado sanidad penitenciaria baina berriro diogu

sí sí muchas gracias presidenta desde el escaño con su permiso bien yo creo que se ha avanzado

lo que se solicitaba lo que entendíamos y que comprobamos en aquella comisión parlamentaria que era una necesidad hoy se va a materializar instando al departamento de salud del gobierno vasco la realización de ese plan de salud penitenciaria para atender y para completar

o esas carencias que todavía se observaban después del análisis especializado completo que hizo

en el ámbito penitenciario en relación con la salud mental o sea el desarrollo de una competencia que ya el gobierno tiene eso es lo que nosotros pedimos efectivamente

el desarrollo de esa competencia en este momento la otra cuestión que se plantea el desarrollo de la competencia general de instituciones penitenciarias

exigible o puede ser atendida o puede ser manifestada pero eso no tiene que hacer que no se desarrolle

el gobierno ya tiene que es la sanidad penitenciaria por eso tan importante es la elaboración de ese plan

las capacidades las competencias sanitarias de salud en el ámbito penitenciario yo creo que ese es el gran avance la otra cuestión pues formará parte de los procesos de negociación

es el desarrollo de una competencia que ya tenemos que es la sanidad penitenciaria en el marco de las personas

itxoin itxoin por puntos pero la transaccional o el texto original

me he equivocado en la primera votación quería votar en contra en lugar de abstenerme
simplemente para que quede claro gracias vale que conste en acta bale oso ondo orain bosgarren puntura pasatuko gara

qué es lo que ha ocurrido en la última hora en la última hora y media y cuál es finalmente el acuerdo que hemos alcanzado entre el grupo popular el grupo nacionalistas vascos y upyd

firmada entre el grupo socialista y grupo eh bildu ha surgido un problema

que parecía que estaba ya definitivamente cerrado y no solamente esto sino que en el desarrollo de los diálogos y negociaciones posteriores entre los diferentes grupos

la votación por puntos ante estos hechos y teniendo en cuenta que queríamos que

ambicioso que recogiera lo fundamental de lo que todos defendemos hemos firmado transaccional donde se recoja todo esto que ustedes mismos posiblemente hayan recibido ya en relación a la enmienda de transacción inicial firmada entre el grupo socialista y el grupo eh bildu en fin el grupo popular veía problemas en el primer punto

y el grupo nacionalistas vascos veía ciertos problemas también en relación a la redacción de los últimos tres puntos y en relación al segundo punto y la propuesta de

esta iniciativa pero los demás grupos y en concreto upyd

el objetivo es mejorar todas las leyes que sean mejorables para que los derechos puedan ser realizables cuanto antes antes que poner en marcha experimentos piloto como el que se planteaba y por lo tanto lo fundamental de lo que hay que hacer en este asunto es reformar la ley nacional

antes pronto va a haber un gobierno socialista entendemos que esta será una de las medidas que tomará sin ningún tipo de dudas en todo caso veremos qué es lo que ocurre como digo hemos firmado una transaccional

lo importante y los principios que defendemos son los siguientes que los permisos de maternidad y paternidad sean más amplios sean iguales sean intransferibles y sean remunerados al cien por ciento creo que esto es algo que compartimos todos los grupos de esta cámara hay que cambiar la ley nacional no valen parches hay que cambiar la ley nacional para garantizar mismos derechos a todos defendemos también igualmente mismos derechos

sin tratos de favor para determinados colectivos o para determinados empleados y defendemos también mismos derechos para todos los ciudadanos

donde vivan esto es lo que al menos yo veo reflejado en esa transaccional y evidentemente también una serie de peticiones al gobierno vasco para que tome todas las medidas necesarias en relación a esta cuestión siempre que se respeten los principios señalados antes creo que hemos hecho

y acuerdo para que finalmente esta transaccional salga a delante gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

más satisfechos que en la primera intervención sí que tengo que decir que lamento que no vaya a poder salir un acuerdo por unanimidad en relación a este punto

al dialogo por parte de este grupo cuando se estaba constatando que había muchos puntos de unión en relación a este asunto de la conciliación

todos los grupos en intentar llegar a un acuerdo yo respecto a la enmienda de transacción que se nos ha presentado por parte de eh bildu

decir que se nos ha presentado en el último momento y por lo tanto

sobre un texto y puntos que también los grupos proponentes consideraban inamovibles

en la que participamos como grupos enmendantes de la que obviamente estamos satisfechos porque creemos que se hacen las cosas como se tienen que hacer se insta al gobierno de españa

sino trayendo a una enmienda al parlamento vasco un acuerdo suscrito en el propio congreso de los diputados por todos los grupos por lo tanto creo que es donde pues se hace fuerza realmente y hace sintonía

que es realmente además al que puede instar al gobierno de españa que es el que tiene la competencia en esta materia la competencia de regulación de los permisos

y de maternidad por el nacimiento cuidado de niños por nacimiento y adopción en ese sentido incorporamos como decía

de la comisión de igualdad en su sesión del diez de octubre de dos mil doce que como digo fue un acuerdo por unanimidad a una propuesta inicial del grupo

al gobierno de españa a abordar en cuanto a la coyuntura económica lo permita y teniendo en cuenta las recomendaciones de la subcomisión

de la vida personal familiar y laboral y la corresponsabilidad la reforma integral de los permisos por nacimiento adopción acogimiento que tenga como objetivos fundamentales asegurar el derecho de la infancia recibir los cuidados por parte de cada uno

de los progenitores en plena igualdad y en su beneficio y en el de todo el núcleo familiar

a compatibilizar el empleo de calidad con la maternidad paternidad sin perder sus ingresos y sin verse privados del disfrute de la vida personal y familiar

que ambos cuenten con el mismo periodo personal intransferible eliminando las disfunciones existentes en la legislación actual

por otra parte también instamos al parlamento vasco a que refuerce todas las medidas en el ámbito laboral para facilitar la conciliación de los menores personas dependientes también que se siga propiciando y se incentive la fórmula del

también a impulsar entre los agentes sociales acuerdos en la negociación colectiva que

y también a tener en cuenta en esas políticas de conciliación los nuevos modelos de familia especialmente

dificultades para simultanear el desempeño de trabajo con el cuidado de los menores por lo tanto desde el grupo popular estamos satisfechos porque se insta al gobierno de españa en los términos en los que

congreso de los diputados y por unanimidad y porque a la vez también le ponemos deberes al gobierno vasco que también tiene competencias en esta materia besterik gabe eskerrik asko

gracias presidenta igual que mis compañeros

señores parlamentarios a mí me gustaría reflejar un poco lo que ha sido el segundo punto que no hemos llegado a ningún acuerdo no entiendo

una situación trabajando junto con emakunde hacen un trabajo analizan una situación de la desigualdad que las mujeres

en la atención a los dependientes que tienen porque efectivamente no sabemos el grado exacto de desigualdad que existe efectivamente creemos

enmienda que transamos con eh bildu podía ser una enmienda que íbamos a tener

con todos los grupos políticos porque realmente nosotros lo que instábamos sobre todo en el tercer punto que en el ámbito de sus competencias del gobierno vasco decíamos el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en el ámbito de sus competencias propicie medidas de flexibilidad en el trabajo para facilitar

para ello seguir participando en otras fórmulas del teletrabajo un teletrabajo que desde luego

lo puso en marcha y está funcionando a día de hoy hay unas ciento y pico personas que están utilizándolo

en los puestos de trabajo aparte de la empresa

se pueda valorar si es posible y puede ayudar a la conciliación nos parece importante promover a los agentes sociales

medidas de conciliación nos parece importantísimo

sino que sea también corresponsable en la empresa privada nos parece fundamental y en todas las políticas de conciliación ante las peculiaridades que presenten nuevos modelos de familia especialmente las monoparentales

para poder simultanear la atención a menores con el desempeño de tareas laborales de formación o búsqueda de empleo en este sentido

un mandato algo que hemos preguntado y queremos volver a preguntar en el pleno monográfico de noviembre del dos mil catorce mi partido el grupo socialista

unas propuestas hizo unos planteamientos en el plan de apoyo de las personas que trabajan en activo o que están en paro qué información tenemos sobre eso no sabemos nada

representante del partido nacionalista me puede contestar

en este plan de apoyo a las personas a los trabajadores sobre todo en paro con cargas familiares creo que sería interesante que nos lo comentase

en comenzar y en poner en marcha políticas públicas efectivas y así poder avanzar pero sin desigualdades no queremos desigualdades

y queremos conciliar igual no queremos las desigualdades que hay todavía existentes y las ayudas se deben garantizar

en las diferentes circunstancias diferentes familias existentes lo debemos tener en cuenta debemos pensar en el presente pero sobre todo en el futuro y abordar las carencias existentes que hay el permiso

de maternidad y paternidad que presenta nuestro partido el partido socialista en madrid

ponen y quieren poner en marcha un incremento de permisos de maternidad y paternidad pasando de las dieciocho semanas actuales a las veintiséis semanas el permiso de maternidad intransferible se ampliará de seis a ocho semanas esto son políticas que pueden ayudar

también equiparamos el permiso de paternidad será de ocho semanas intransferibles las disfrutarán las diez semanas restantes serán opcionales entre padres y madres por lo tanto

estamos trabajando sobre la equiparación y sobre las necesidades de una ciudadanía de una sociedad que todavía

bastante importantes pedimos que se trabajen medidas para facilitar la conciliación y la atención de menores personas dependientes también en la empresa privada con los agentes sociales se debe trabajar y acordar

deben existir acuerdos en la negociación colectiva que promuevan medidas

y pedimos que haya voluntad de empezar a dar pasos para revertir esta situación muchas gracias eskerrik asko fresno andrea

la señora fresno decía que teníamos miedo hacer unproyecto piloto

no es miedo es ser consecuentes porque decía la señora etxeberria no nosotros estamos solamente marcando

cuando hay un montón de opciones al respecto sí sí sí y nosotros creemos que quienes tienen que decidir qué proyecto se va a hacer o no y en qué dirección

son los agentes responsables de tomar ese tipo de decisiones porque en base a qué se decide que el modelo islandés es el mejor

que por cierto no se paga al cien por ciento en el islandés no es miedo nosotros somos consecuentes y sabemos cuál es la forma y cuál es el modo y de ahí venía nuestra enmienda vuelvo a repetir como he dicho en el primer tiempo que estamos en un tenemos un ámbito jurídico amplísimo está abierto totalmente por lo que está pasando en madrid por lo que tenemos entre manos aquí en el parlamento

eficaces y realistas y si podemos que es lo que queremos también progresistas porque lo que queremos todos y todas aquí es la equiparación besterik ez eskerrik asko

la solución justa y definitiva del conflicto del sahara occidental

el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante la celebración del referéndum denunciamos el expolio de los recursos naturales en el sahara occidental

y a los derechos de la población saharaui consideramos necesario a la vista de la grave situación que se vive en el sahara occidental que la minurso funciones y cometidos por ello instamos a naciones unidas a que dote a la misión

políticas necesarias encaminadas a lograr una solución justa y definitiva en defensa de legítimo derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación mediante un referéndum libre y regular

inacabado priorice como miembro del consejo de seguridad de naciones unidas las cuestiones relativas al cumplimiento del plan de paz para el sahara occidental y promueva

y actúe en el mismo sentido en su participación en el grupo

hiru tratar inmediatamente a mumia abu jamal con los nuevos fármacos

para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión del alto comisionado de derechos humanos de las naciones unidas eta lau